muchas gracias señora presidenta señorías

pues otra vez estamos aquí con el debate lingüístico señor isasi

venimos a hablar de un problema que sí que efectivamente creemos que afecta

en muchas familias que se encuentran con este problema

la normativa autonómica que regula las exenciones

en cualquier centro de la comunidad autónoma vasca procedente de otros sistemas educativos de fuera de euskadi que no tengan conocimiento de euskera

la asignatura del euskera en nuestra comunidad y solamente estarán exentos de hacerlo exentos de su evaluación durante dos años y prorrogables excepcionalmente hasta un máximo de cuatro eso es lo que dice hoy esta normativa no tiene en cuenta las circunstancias del nivel educativo al que se ha incorporado el sistema educativo vasco independientemente de si se incorpora

o que en primaria no tiene en cuenta las circunstancias familiares no tiene en cuenta efectivamente si estamos ante un estudiante

su capacitación para los idiomas no se tiene en cuenta nada de esto no se tiene en cuenta las dificultades de aprendizaje o si su familia está desplazada temporalmente o no

para estar por un periodo temporal por una cuestión de desplazamiento laboral de sus padres no lo tiene en cuenta

los niños son capaces eso lo sabemos bien todos no todos los niños son iguales no son todos capaces de aprender el euskera en dos años

por eso la exención del euskera a nuestro juicio lo hemos dicho muchas veces en esta comunidad supone una necesidad para aquellos niños que provienen

cuando llegan aquí es una necesidad para ellos que se arbitren medidas como esta de la exención porque de otra manera condicionaríamos gravemente sus estudios o sus opciones universitarias porque llagando a euskadi y matriculando a sus hijos

con que están obligados a presentarse en el bachillerato

a la evaluación de euskera y a la selectividad de la prueba de euskera eso es lo que se encuentran

estamos condicionando sus perspectivas de futuro sus perspectivas universitarias y efectivamente eso puede suponer claramente una pérdida una limitación de sus opciones

por tanto es una necesidad especialmente

a nuestro juicio sería flexibilizar esa concesión de la exención tanto

para el mayor número de supuestos posibles para evitar

aunque estemos hablando de pocos casos como esta mañana se refería el señor isasi aunque hablemos de pocos casos en este caso

a supuestos que efectivamente pueden dañar gravemente los derechos de las personas y sus oportunidades

a los alumnos que se incorporan a estudiar en nuestra comunidad que vienen de fuera pues el departamento de educación publicó en el boletín oficial

que regula esa exención y se adjunta

cada curso y aunque se tiene en cuenta entre otros factores el nivel educativo al que se incorpora el alumno en todo caso dicha regulación persigue que el mayor número del alumnado siga la enseñanza del euskera como es natural

y finalmente lo que ha terminado aprobándose en el congreso de los diputados se menciona repetidamente que la regulación de la exención para la exención de la lengua oficial para cursarlo o incluso tiene que ser establecida por la normativa autonómica y deja este campo

efectivamente al arbitrio de las comunidades autónomas

a la educación infantil si un chico viene aquí se incorpora en los primeros cursos en la educación infantil en primaria no hay exención posible a los chicos que vienen de fuera las familias que vienen de fuera con chicos pequeños chicas pequeñas

independientemente de que sus padres vayan a estar aquí muy pocos años un número limitado de años en ese momento la normativa les exige hacer un planteamiento de inmersión lingüística como a cualquier otro

denegadas las solicitudes de exención de la evaluación de la enseñanza en los siguientes casos cuando se solicite la exención infantil y para el primer ciclo de educación primaria

a la educación secundaria como les decía solo se permite una exención por dos cursos con una prórroga excepcional de dos años más bien esa exención de evaluación en la enseñanza obligatoria resulta que lleva a

en primero de bachillerato se encuentra de narices con la obligación

de evaluaciones en euskera cuando sus compañeros vienen cursando la asignatura del euskera desde hace catorce años y ellos se encuentran con que todavía no la han cursado traemos este asunto aquí porque efectivamente hoy

de un caso que tuvo repercusión en los medios de comunicación y puesto que esta mañana también hemos tenido la oportunidad de escuchar algunos casos

mostrar ante ustedes en esta cámara

el último caso que ha tenido en los medios de comunicación de esos pocos que se atreven a salir a la luz

en dos mil cinco que finalmente en dos mil ocho puede traer desde colombia a sus hijos a vitoria

a vivir con ella escolariza a sus hijos en un centro educativo se le traslada al parecer erróneamente pero

y no conocer el euskera quedaron exentos de estudiar euskera hasta que este pasado curso

que sus hijos tienen la obligación van a ser evaluados del euskera este año bien

de que se le exija a sus hijos

de que sus hijos puedan responder a esa exigencia perdón ante esta

gravemente el futuro de sus hijos efectivamente sus calificaciones del bachillerato se limita sus oportunidades a la hora de presentarse en igualdad de oportunidades a la selectividad con el resto de sus compañeros

va a pedir ayuda a las administraciones públicas se dirige a la delegación de educación y nos dice

que la respuesta de la administración vasca cuál es oiga pues esto es lo que hay

esto es lo que le dicen en la delegación de educación no son capaces

singular para un caso concreto le dicen oiga coja a sus hijos

se llama limitar los derechos fundamentales de las personas no otro no que una señal de tráfico esté en euskera o en castellano

esto que cuando llegas a la delegación de educación y tienes un problema independientemente de cuál sean las causas tienes un problema grave que te encuentras

saben ustedes cuántos hijos de familias vascas

en castro cuántos cuántos lo hacen en logroño también hijos de familias de oyón y de pueblos de la rioja alavesa muchos

a llevar a sus hijos a estudiar fuera de nuestra comunidad ante la falta de respuesta de la administración y nosotros venimos aquí no con un grave problema no a modificar la política lingüística

a reclamar simplemente que para casos excepcionales como este

soluciones específicas simplemente venimos a decir eso que

flexibilidad que cuando estamos hablando de los niveles superiores de la educación se pueda entender que la administración tiene que prever que no todo el mundo se encuentra con las mismas

no todo el mundo tiene las mismas dificultades hay algunos que las tienen añadidas

también a esas familias y por eso creo y traemos esta proposición no de ley para terminar

que obliga a las familias a tomar esa difícil solución decisión difícil decisión de llevar

de decidir que sus hijos ya no pueden formar parte de nuestro sistema educativo

porque la educación vasca ha puesto otro tipo de objetivos entre sus prioridades y la educación de los niños que en este caso estaban exentos del euskera ya no forman parte de las prioridades de la administración y la respuesta fácil es oiga váyase usted a estudiar a miranda de ebro nosotros creemos

que es tremendamente fácil buscar una fórmula para dar una flexibilidad a los decretos que fijan la normativa de exenciones flexibilizar para que

la puedan disfrutar de manera indefinida y no

con esa limitación en el bachillerato y afecte de esa manera a su futuro universitario

es desconsiderado por la normativa de exenciones como usted ha dicho

a la regla son la excepción los casos son escasísimos pero los hay ciertamente si alguien en una ventanilla dijo a alguien

a miranda de ebro mal dicho pero si algunos alumnos

se niegan a ser escolarizados a recibir

en euskera mal hecho también mal hecho por lo tanto hay que dar soluciones específicas a la casuística específica

una modificación que nosotros introdujimos también en el decreto porque

como ustedes bien saben decía que todo niño o niña que ya llegara en primaria

claro toda la política lingüística ha venido avanzando el texto nuevo

decreto dice así de acuerdo con lo establecido en la ley diez barra ochenta y dos

o que justifique debidamente su residencia no habitual en la comunidad autónoma del país vasco

o evaluación introdujimos estos dos conceptos porque no queremos que nadie sea eximido de la enseñanza salvo casos muy muy muy muy excepcionales

o llegar realmente en primero de bachillerato muy muy excepcionales por lo tanto una cuestión es

y otra cuestión es ser eximido de la evaluación durante undeterminado tiempo por lo tanto nosotros lo que hicimos fue fomentar que el alumno estuviera en la enseñanza del euskera

número de alumnos siga en la enseñanza del euskera se tendrá

el nivel educativo al que se incorpora el alumno o alumna su historial académico y las características socio lingüísticas del entorno por lo tanto la ponderación

y hay un limite y es que efectivamente esa persona pueda estar en riesgo de no poder seguir sus estudios

y se encienden las alarmas rojas de los profesionales es que

ahora bien este hecho no implica que la persona

que tiene que trabajar en dos lenguas cooficiales quede exento automáticamente de la enseñanza del euskera hay que ir acompañándole con planes individualizados sí por qué otra cosa son los prl

qué otra cosa son todos los servicios de educación la inspección educativa para determinar las circunstancias atinentes a cada caso y esto es fundamental

sin embargo si usted lleva un niño de la misma edad a una zona socio lingüística en la que no se hable el euskera ciertamente va a necesitar mucho más respaldo de la escuela pero es que la escuela tampoco puede hacerlo todo

en toda esta tarea de la normalización lingüística vamos a decir de la recuperación lingüística porque nunca hubo tantos hablantes nunca hubo tantos conocedores del euskera

la escuela es crucial pero la escuela no debe hacerlo todo no puede hacerlo todo y esto lo sabe cualquier lingüista y la escuela ha venido haciéndolo todo

vaya incorporándose y fortaleciéndose con el habla con el uso

todo porque es verdad que la escuela formaliza el pensamiento y por lo tanto requiere de la palabra requiere del lenguaje pero el fin de la educación no es el conocimiento lingüístico

la lengua es fundamental la lengua no solamente es comunicación

la lengua es símbolo la lengua es característica la lengua es patrimonio y la lengua configura pensamiento

el fin de la educación no puede ser por importante que sea la lengua exclusivamente el enseñarnos lenguas por tanto aquí hay que establecer una ponderación de tal manera que efectivamente se enciendan las alarmas pero la normativa como está salvo que se aplique de manera desmesurada nos podría valer nos puede valer

automáticamente ya que sea dejado exento

y en seis años se puede aprender una lengua y más a esa edad entonces

por eso es importante la ponderación y quién tiene que hacer esa ponderación

qué es lo denunciable de lo que usted nos dice pues que vaya una ventanilla de la delegación y que le digan que se vaya a otro país eso es denunciable

yo tengo que coger a ese niño y ver sus peculiaridades conocer las características del caso y atender conforme porque yo soy un servicio público y atender conforme a sus necesidades pero no le voy a tolerar

si yo además le voy a permitir que no sea evaluado hasta que no adquiera un nivel razonable por qué no entonces yo creo que ahí hay que congeniar ambas cosas a mí me parece

me parece que hablar y criticar y comentar las políticas lingüísticas es democrático en un país democrático todo es objeto de crítica todo es cuestionable

y yo creo que realmente en fin en la educación

lo que usted quiere hacer bien pero sin permitir que aquellos que se quieran escapar por los márgenes puedan escaparse porque también existe gente y usted estará de acuerdo conmigo

yo me pongo el uniforme y digo que aquí yo no tengo por qué esto que estoy de paso

dónde está de paso entonces la configuración del sistema educativo vasco

lo respetamos cada vez que lo votamos aquí democráticamente la mayoría votamos eso y lo que hay que hacer sí es cuidar que

excelencia con mucha ponderación de tal manera que

nada más y muchas gracias y desde luego yo creo que el departamento de educación estará atento también a las circunstancias de este caso

de evaluarles de euskera condiciona gravemente sus estudios e incluso sus opciones universitarias ya que deben afrontar la prueba de euskera en la aún vigente prueba de selectividad hau da zuk hona

porque está planteando lo que es

ari zarela por lo tanto no nos tome el pelo lo mismo que usted le ha dicho esta mañana al señor isasi balanzategi y no utilice dos varas de medir señor oyarzabal eta egin duzun beste argumentazioa esan duzu

que yo creo que es de respetar pero de ahí a veinte metros tiene otro que usted no le ha preguntado su situación tiene otro caso colombiano de una persona venida a euskal herria con sus padres

sabe lo que está diciendo lo que está diciendo es

ondo ikusten exentzioa ematea que se arrepiente de ello ella por qué porque ha sido un gran error interpreta que ha sido un gran error darle esa exención a una persona que vino aquí de colombia

y que se ha incorporado y que vino aquí a nuestra tierra

tienen que venir de nafarroa a araba porque su partido no les posibilita que puedan estudiar

allí por lo tanto no sé si nos está tomando el pelo o no pero lo que si está claro es que usted utiliza dos

celaá andrea esaten duzuenean evitando que nadie quede excluido de sus posibilidades de formación futura nadie queremos eso

araudia aplikatzen jarraitzea con la debida ponderación

zuk gobernu ardurak izan dituzu eta con la debida ponderación esateak eta un brindis al sol badakizu gauza

bi mila hamareko dekretua eta horri erreparatu diozu eta horri erreparatu nahi diot nik ere y en este decreto señora celaá no solo cambió y quito del decreto eso que últimamente

fueron algunos euskal herrias exagerados como decir

no solamente quitó eso modificó totalmente la disposición final segunda del decreto del dos mil siete que planteaba la clarísimamente

quiénes tendrían exención de la evaluación de lengua vasca y literatura aquellos que su escolarización en el sistema educativo vasco

desde un punto de vista educativo el consejo no considera conveniente la exención

al máximo este tipo de exención para ello será necesario aplicar las modificaciones curriculares y dotar los recursos

cuando el consejo le planteaba eso hauxe da celaá andrea zuk utzitako herentzia

eta hau galdetzen dizut zure osoko zuzenketak horixe esaten duelakoeta esaten duena da que se apliquen los criterios que estableció la señora

uno de los hitos importantes en este recorrido ha sido el proyecto del currículum vasco que se caracteriza por ser una iniciativa conjunta de los agentes educativos sociales y políticos que consensuan en un modelo educativo y curricular propio este modelo educativo

en distintas propuestas de los agentes educativos sociales que sirvieron de base para la formulación del decreto por el que se establece el currículum de la educación básica en la comunidad autónoma del país vasco decreto del dos mil siete

zera esaten da salbuespen inguruan hemen aipatu den bezala se dice que de acuerdo con la ley

en un sistema educativo distinto al sistema educativo vasco y en el que no esté incluido

y literatura o que justifique debidamente su residencia no habitual en la cav podrá ser eximido de la enseñanza o la evaluación

el departamento lo determine en todo caso en dicha regulación que se buscará el mayor número de alumnos

sigan aprendiendo euskera y que se tendrán en cuenta entre otros factores como el nivel educativo al que se incorpora el alumno o la alumna su historial académico

etcétera por tanto señor oyarzabal es mentira que no se tenga en cuenta las circunstancias personales de cada uno de los alumnos y alumnas

porque consideramos que con carácter ordinario es suficiente el periodo de dos cursos para que el alumno o la alumna

cursar la materia en el curso y en el modelo lingüístico en el que esté escolarizado además la concesión de la prórroga excepcional

en el que no hayan sido capaces de llegar a esos niveles

otra cosa bien distinta es que haya quien quiera hacer creer a una determinada parte de la sociedad que el euskera es el problema con mayúsculas el único problema

y usted sabe que el alumnado que llega al sistema educativo vasco venga de donde venga si ha tenido una escolarización continuada tiene unos hábitos de estudio

puede afrontar sus estudios con normalidad con esfuerzo y trabajo como todos pero con normalidad también en lo relativo al aprendizaje del euskera

evaluación pero como la administración es consciente le vuelvo a repetir que hay una segunda posibilidad de solicitar

flexible y que se tienen en cuenta todas las circunstancias entendemos que el gobierno vasco incumpliría el mandato que le dicta la ley de normalización del uso del euskera si no adoptase las medidas encaminadas a garantizar

adquiera un conocimiento práctico suficiente en ambas lenguas oficiales eh bilduren zuzenketari dagokionez zuzenketan esaten diren hainbat konturekin

para con el señor oyarzabal yo le preguntaría si usted sería capaz de presentar una proposición no de ley en este parlamento instando al gobierno vasco

porque un alumno o alumna ha llegado al sistema educativo vasco

porque no todos los alumnos que llegan al sistema educativo vasco saben castellano vienen de muchos lugares y bien distintos a que no nos trae una proposición no de ley eximiendo del conocimiento de la evaluación del castellano en el sistema educativo vasco no

con la otra lengua oficial de este país koherenteak

votaremos a favor de la iniciativa original porque a nosotros nos parece que es una reivindicación procedente justa y necesaria votaremos a favor de ella porque además lo que se propone

de que se pueda aplicar y de que se pueda hacer yo creo que es una propuesta que trata de salvar determinadas injusticias que se han venido produciendo en los últimos años por lo tanto yo creo que ninguno de esta cámara debería de estar perjudicado o preocupado

esa normativa se modifique en los términos que plantea el grupo popular nadie debería estar preocupado ya digo que me parece una propuesta perfectamente razonable poder liberar a los alumnos que vienen de otras comunidades autónomas de la carga que les puede suponer evaluarse me parece completamente razonable poder liberar y que efectivamente se libere cosa que no ocurre en todos los casos obligarles a evaluarse de un idioma con el que no han estado nunca en contacto condiciona

es una injusticia se perjudica a determinados ciudadanos se perjudica a determinados jóvenes no se piensa ni en su presente ni en su futuro ni en su futuro personal ni en su futuro académico no se tienen en cuenta sus circunstancias personales académicas o familiares no se tienen en cuenta sus circunstancias personales

o al menos no en todos los casos porque en los últimos tiempos ya se ha expresado aquí ha habido determinados casos que han provocado determinadas injusticias se condiciona gravemente por lo tanto el presente y el futuro de la gente por lo tanto me parece razonable

pero el daño que se provoca en esos pocos casos

nos parece razonable que esto se modifique el señor oyarzabal hablaba de un caso concreto evidentemente ha habido otros y hay otros yo mismo tuve que hacer labores de intermediación entre un chaval saharaui y el propio departamento de educación para que se pudiera

un chaval saharaui apoyado por sus propios profesores y que sin embargo el departamento de educación injustamente la espalda y como él ha habido otros por lo tanto basta con modificar la normativa no veo yo cuál es el problema qué problema hay en introducir cierta flexibilidad para impedir

o ninguna injusticia se produzca por qué vamos a tener confiar

a modificar la normativa de tener una normativa lo suficientemente clara que no provoque injusticias nunca ya digo basta por lo tanto modificarla la enmienda de transacción que ustedes han firmado nos llama poderosamente la atención porque se plantea continuar aplicando la normativa que regula

con la debida ponderación y yo entiendo que cuando se dice con la debida ponderación se está diciendo que con cuidado y cuando se dice que hay que aplicar una determinada normativa o una ley con cuidado es

que esa normativa o esa legalidad vigente puede dar lugar a determinadas injusticias porque ustedes también conocen casos concretos de personas que no han podido ser liberados de

y viene a decir que con cuidado es decir consideran ustedes que esta normativa no es del todo correcta

provoca injusticias decía la señora celaá que la normativa nos puede valer y ya digo

esta normativa no ha valido en todos los casos ha provocado determinadas injusticias y no veo que sea tan complicado modificar esta normativa para impedir que haya cualquier tipo de injusticia y luego evidentemente no se ha insistido mucho en este asunto pero claro luego está también

que prefieren no venir a euskadi como consecuencia de que existe esta normativa y otras normativas y otras leyes relacionadas con la imposición del euskera

no solamente que se va a estudiar fuera de euskadi sino que incluso definitivamente de euskadi como consecuencia de todo este cúmulo de normativas y leyes injustas en definitiva creo que es un tema muy sencillo de entender es una propuesta razonable es una propuesta justa y por lo tanto nosotros votaremos a favor de ella

muchas gracias señora presidenta como esta mañana nos han leído

leer la carta que envió a todos los partidos y al ministro de educación en este caso

que se llama marcela y que dice así soy colombiana pero también tengo nacionalidad española

dos mil ocho al comienzo del curso escolar pude traer a mis tres hijos que tenían entonces catorce doce y once años

me comunicaron que no solo tenían que estudiarlo sino que también iban a ser evaluados de esa asignatura el mayor que estudiaba segundo de bachiller

calló en una depresión dice que

no aprobó el curso el segundo aprobó el curso le dieron el título de secundaria

sin la posibilidad de seguir estudiando en el país vasco porque dijeron no tiene aprobada la asignatura de la lengua vasca

nada al euskera el hecho de que mis hijos que la desconocen porque obviamente no la hablamos en casa y porque tampoco se oye en la calle no la dominen

además en un futuro próximo es posible que regresemos a colombia o por razones laborales de mi marido posiblemente tengamos que

puede ser trasladado por motivos de trabajo he recorrido todas las oficinas de educación del gobierno vasco donde me dicen que la ley es la ley

a treinta y cinco kilómetros de mi domicilio he enviado cartas a todos los partidos y sindicatos

también a ese ministerio sin obtener hasta hoy ninguna solución también acudí al defensor del pueblo vasco al ararteko que me acaba de contestar que

a más prórrogas y el no puede incoar ningún expediente ahora mismo

en el mismo centro de vitoria en el que venían haciéndolo no están inscritos estamos en septiembre y mis hijos no tienen ningún centro al que acudir

luego ya llegamos al párrafo en el que se despide estamos ante un caso que resume también otros muchos casos

pero casos que efectivamente requieren una atención específica porque señora celaá no estamos ante una persona que

vive en vitoria con un entorno sociolingüístico específico

y no llega con niños de dos años que con cuatro van a saber hablar euskera

luego realmente aquí estamos ante casos diferentes que no se atienden de manera diferente no se atienden a las dificultades de aprendizaje de los chicos porque no estamos ante

a esa exigencia sino que tienen además dificultades añadidas en el aprendizaje

luego no estamos hablando aquí que la normativa pueda permitirnos a día de hoy una flexibilidad suficiente como para atender los casos específicos luego la pregunta que nos hacemos hoy es una persona que solamente ha estudiado dos años en euskera porque nosotros

de la evaluación por supuesto que mantenemos que se les haga un planteamiento de aprendizaje claro y

justa y razonable pero nosotros planteamos exención no en el aprendizaje

creemos creen ustedes señorías que un chico con dos años de euskera que viene de otra comunidad que no lo conoce que no lo hablan en su casa ni en su entorno social es posible creo que es lo que tenemos que pensar el pnv nos ha dicho que sí que es posible

nosotros pensamos que no en las mismas condiciones que sus compañeros con dos años de euskera puede presentares un chico en el bachillerato con las mismas opciones que sus compañeros

creemos que no seguramente habrá algunos que si que lo puedan hacer que lo puedan conseguir seguramente hay algunos incluso que sus familias tengan la oportunidad

otras fórmulas complementarias a la de la escuela para que se puedan poner al día y alcanzar determinados niveles en euskera pero creemos que pueden nosotros creemos que no creemos que el futuro desde luego de muchos jóvenes se pone en riesgo

creemos que no se debe avanzar así no se debe avanzar así porque creemos que esto exige simplemente una reflexión nosotros estamos convencidos señora celaá termino ya presidenta estamos convencidos

que viene a dar carpetazo a aquella del dos mil siete que efectivamente a nuestro juicio condicionaba claramente

las oportunidades de muchos jóvenes la normativa del dos mil siete es suficiente

mejora la de dos mil siete pero no nos podemos permitir en el dos mil trece mejorar la del dos mil diez

efectivamente buscar una fórmula flexible que permita sobre la normativa del dos mil diez arbitrar una solución

creemos que no es necesario importunar a nadie no es necesario condicionar la vida de nadie

es que señor oyarzabal la normativa de dos mil diez le da a usted campo suficiente para poderlo hacer le da a usted campo suficiente

evita los elementos negativos reactivos en contra de una política que ha de ser progresiva

flexible y que esos son los principios democráticos precisamente porque usted recordará que norbanakoaren borondatean

menderatzea bai como usted ha puesto en su propuesta pero es que en la propuesta no estamos hablando del marco general

son las excepciones y por lo tanto efectivamente la modificación que se hace en la disposición en la modificación que se hace en el decreto de dos mil diez a este respecto

sin negar lo que es el talante para que todo el mundo aprenda sino al revés propiciándolo y el consejo escolar de euskadi lo que dice es procúrese que todo el mundo esté en la enseñanza del euskara no sé para que me lo trae a colación porque lo he dicho yo en mi primera intervención y eso es justo lo que hace la norma

entre enseñanza y evaluación todo el mundo en la enseñanza oiga y en la evaluación razonablemente esté en disposición de hacerla usted cree que la disposición del dos mil siete donde sí o sí a los dos años en cualquier nivel a un alumno hay que incorporarle al examen oficial eso hace más euskaldunes usted cree la verdad es que es una cosa increíble e incoherente que creyendo eso es decir creyendo que efectivamente el voluntarismo la imposición

completamente es como incoherente entonces

ciertamente en todos nuestros principios democráticos de la política lingüística

el avanzar con consenso con acuerdo de una manera progresiva de una manera flexible pero obviamente no indiferente

y si la política lingüística en el país vasco ha podido avanzar y no así en otros muchos sitios es porque ciertamente

asumir una lengua que no era materna los esfuerzos que ha tenido que hacer hansido una especie de presión social aceptada es decir

hemos estado a favor los padres y madres que eligen modelo quinientos están a favor

pero tenemos que cuidar mucho que esa presión social aceptada no se convierta en una opresión y para eso por eso todos los que legislaron anteriormente

hablan de consenso de acuerdos de la importancia de la relacción activa positiva

avanzar con acuerdo y de manera flexible y eso es justamente lo que nos parece es el marco adecuada para tratar con la excepción y con respecto a las ponderaciones

hasta el código civil no quiere decir simplemente que realmente lo tenemos que hacer con cuidado una ponderación quiere decir un tener en cuenta una acomodación

usted tendrá que tener en cuenta tendrá que ponderar tendrá que medir tendrá que acomodar

claro si la aplicación se hace de una manera brutal pero la aplicación

por lo tanto denúnciese aquellos casos en los que realmente ha podido recaer de una manera injusta entrecomillada

para poder hacer que esos alumnos y alumnas terminen con éxito

oyarzabal jauna sinesmenetaz ari yo creo que no consiguen en dos años y yo creo que si que consiguen en tres y yo creo que a ver esto no es un mundo de creencias

esto aquí lo que estamos diciendo es que una persona venida de fuera con un programa con un trabajo individual con recursos de dos años lo que estamos diciendo que se va hacer un recorrido con ellos y eso es un trabajo a los especialistas y a los expertos de la educación cómo se hace eso no ve venga a decir que yo creo que no se aprende o que se aprende es decir que bagaje experto tiene usted

de lo que es no la política educativa sino lo que son cuestiones profesionales que les corresponden a los profesionales de educación y usted no les ha preguntado

por lo tanto no es una cuestión de creencia es una cuestión de que se desarrolle un programa

con el objetivo señor oyarzabal de que adquieran las competencias suficientes en euskera como en castellano

eta alderdi sozialistari dagokiona no me hable

del decreto dos mil siete sabe usted qué fue consensuado con todos prácticamente todos los agentes educativos lo sabe entonces qué me habla de imposición y de voluntarismo es decir este tema

producto del acuerdo que se hizo con todos los agentes educativos cuestión que usted cuando modificó el decreto de dos mil diez no acordó con nadie

por lo tanto vamos a ser un poco serios vamos a ser un pocos serios y esto lo veían señor oyarzabal

todos los agentes educativos veían que sí era factible llevar a la practica para los que no estuvieran un año aquí exención pero para el resto un programa de trabajo individual en los centros con recursos acordado con todos los agentes educativos por lo tanto señora celaá no le admito que me hable de imposición que me hable de voluntarismos besterik ez eskerrik asko

bai eskerrik asko legebiltzarburua nuestro grupo no ha hablado de ningún caso concreto

menores de edad usted sabe que yo he manifestado en más de una ocasión

de hablar de cuestiones de menores concretos con nombres y apellidos perfectamente identificados que usted tiene costumbre de traer a la comisión y hoy lo ha hecho a este pleno a hecho un gran esfuerzo por contarnos únicamente aquello que creía que podía reforzar su tesis

todo lo demás y yo también lo voy a obviar por responsabilidad pero si me permite quisiera hacer un comentario a esa carta usted ha leído mis hijos estaban exentos de estudiar euskera no no no sus hijos no estaban exentos de estudiar euskera estaban exentos de ser evaluados de la lengua

no de estudiar euskera por tanto la persona que ha escrito esa carta ya

tiene un error en el concepto le vuelvo a decir que el alumnado que llega al sistema educativo vasco con una trayectoria académica con hábitos de estudio con un entorno social y familiar que propicie el estudio aprenderá también euskera todas las asignaturas pero también aprenderá euskera y si no lo consigue en dos años el centro atendiendo a sus circunstancias personales podrá solicitar una prórroga y le puedo decir que hasta la fecha todas las peticiones que han hecho los centros

teniendo en cuenta esas circunstancias que tanto le preocupan a usted no podemos aceptar esta propuesta porque es cierto que la ley posibilita las exenciones

podemos ir en contra de ese principio general las exenciones son una excepción pero el principio general es que todos los alumnos y las alumnas aprendan también la lengua que no han elegido como lengua vehicular

no me ha contestado y me gustaría en algún momento nos pudiera decir si usted

gracias presidenta es e i te be objetiva independiente imparcial y veraz lo ha sido alguna vez de la historia han sido y son habituales las quejas de unos y de otros partidos políticos en relación a su labor nosotros pensamos que no y por lo tanto nuestra obligación es tratar de tener un ente público que sea profesional objetivo independiente

que tenga calidad y que sea imparcial y puesto que no renunciamos a tratar de lograr estos objetivos

esta proposición no de ley en nuestra opinión a día de hoy tenemos un sistema que no garantiza el mérito y la capacidad suficientes ni del director general ni de los miembros del consejo de administración de e i te be el propósito de nuestra iniciativa es impulsar las reformas legales que sean necesarias para garantizar los objetivos que he señalado antes profesionalizar el ente y garantizar su independencia respecto de los partidos políticos

de administración obedecen a razones partidarias que lastran e imposibilitan en gran medida el cumplimiento riguroso de los principios que deben presidir

radio televisión vasca la profesionalidad la objetividad la independencia la veracidad la calidad y la imparcialidad de las informaciones

esta proposición no de ley y proponemos que este parlamento inste al gobierno vasco a realizar

para por un lado modificar el procedimiento de elección del director general de e i te be de tal forma que se garantice su independencia

y planteamos un procedimiento por un lado la convocatoria pública de la plaza la preselección de los candidatos con criterios objetivos

de e i te be puesto que obviamente es un ente público y aprobación por consenso o en su defecto por las tres quintas partes de los parlamentarios del director general y con un número mayor de parlamentarios a favor que en contra y por otro lado

modificar el procedimiento de elección también de los miembros del consejo de administración de e i te be de tal forma que se garantice su independencia y que la ocupación de dichos puestos estén basados realmente en el mérito y la capacidad y planteamos también aquí un procedimiento concreto

la preselección de los candidatos con criterios objetivos basados en criterios mensurables comparecencia y examen de los candidatos en la comisión parlamentaria de control de e i te be

por consenso o en su defecto por las tres quintas partes de los parlamentarios de los miembros del consejo de administración y con un número mayor de grupos parlamentarios a favor

y proponemos también al gobierno vasco impulsar todas las modificaciones legales que sean necesarias para que podamos tener cuanto antes una e i te be que garantice estos principios señalados antes máxima profesionalidad objetividad independencia veracidad calidad

del ente público radio televisión vasca que e i te be sea un ente público

al servicio del partido político que gobierna sea este cualquiera de los presentes o cualquier otro

que es algo que históricamente a ocurrido que e i te be esté al servicio del partido político que gobierna

que habitualmente exigimos y de ahí nuestra pnl pretende por lo tanto garantizar objetivos que todos los presentes décimos compartir y reivindicar pero que creo que es una buena oportunidad plantear esta iniciativa para comprobar finalmente cuales de los grupos parlamentarios aquí presentes quieren realmente garantizar esos objetivos y cuáles no zein da ekimen honen xedea helburua

con otras televisiones públicas autonómicas o con la propia radio televisión española convertidas muchas de ellas o prácticamente todas en radios y televisiones de partido en correas de transmisión del partido político que gobierna

al servicio del gobierno de turno en utensilios tergiversadores de la realidad y que pretenden vender a la sociedad

en lugar de otras por lo tanto en este punto podríamos poner muchos ejemplos de otras televisiones autonómicas que en absoluto cumplen estos principios que hemos enunciado en varias ocasiones no es por lo tanto un asunto que

ni mucho menos sino que ocurre en otras televisiones autonómicas en la propia radio televisión española incluso en otras muchas televisiones autonómicas ocurre

mayor gravedad digamos de lo que ocurre en e i te be y por lo tanto esta es una iniciativa que la defendemos aquí en el parlamento vasco pero que la hemos defendido allí donde tenemos representación en las diferentes instituciones

el partido nacionalista vasco y el partido popular no han presentado enmienda

no sé exactamente qué es lo que harán si votarán a favor de esta iniciativa

de esta iniciativa y si ustedes votan en contra de esta iniciativa entiendo que

y de los consejeros del consejo de administración es el apropiado en fin ustedes están en su derecho de defender esto pero yo creo que somos muchos los que compartimos la idea que e i te be a día de hoy no cumple esos requisitos

algo tendrá que ver la forma de elección del director general de e i te be y la forma de elección de los miembros del consejo de administración nosotros queremos

este hecho y por lo tanto planteamos esta iniciativa no basta con quejarse en este parlamento o en la comisión de ayer en relación a cuál es el trabajo que habitualmente realiza e i te be sino de lo que yo creo que se trata es de plantear las modificaciones legales que sean necesarias para corregir estos hechos

durante toda la historia en fin nosotros

sin ningún tipo de problema que ustedes no consideren apropiado el sistema que upyd propone nosotros esto podemos comprenderlo lo aceptamos sin ningún tipo de problema pero nos gustaría saber cuál es su propuesta alternativa si es que la tienen lo que realmente ocurre es que ustedes defienden el sistema actual también están en su derecho de defender este sistema actual faltaría más pero ya digo e insisto en que

que ustedes no consideren apropiado el sistema concreto y exacto que upyd plantea pero nos gustaría preguntar también preguntarles a ustedes si tienen algún otro sistema

la veracidad la objetividad la pluralidad en el ente público e i te be lo digo además porque en las últimas horas en los últimos días ha habido varios grupos en esta cámara que han

a e i te be por no cumplir estos principios por lo tanto habrá que saber cuáles son las soluciones que estos grupos plantean en fin esta es por lo tanto iniciativa una iniciativa concreta una iniciativa clara que trata de mejorar el funcionamiento de e i te be de hacerla más objetiva y que todos estos objetivos se cumplan cuanto antes yo creo que e i te be

lo mismo ocurre e insisto en otras televisiones autonómicas de hecho en algunas televisiones autonómicas diferentes a e i te be

la utilización que se realiza de ellas por parte de los partidos políticos que gobiernan en distintas comunidades autónomas creo que ustedes y yo mismo podemos estar de acuerdo en esto lo que se trata es de impulsar los mecanismos para cambiar que no sea solamente quejarnos amargamente de lo que ha venido ocurriendo sino de plantear fórmulas novedosas ya existentes en otros lugares para poder lograr

y por tanto la existencia de una pluralidad de prestadores autónomos que pongan a la disposición del público una oferta de contenidos audiovisuales diversa

muchas gracias presidenta señorías señor maneiro el partido popular defiende una

que cumpla con los objetivos marcados como servicio público como un servicio público de calidad

de profesionalidad de objetividad de independencia de veracidad y de imparcialidad las informaciones

nosotros queremos una e i te be que sea de todos

nosotros desde luego queremos una e i te be así

cumple esos objetivos que no responde a esos principios las actuaciones de la casa pero realmente

traer aquí una proposición no de ley que

quiero que se moleste pero es que me parece inverosímil la propuesta que ha traído aquí la verdad que el planteamiento que nos hace casi nos podría traer una proposición de ley

nos trae a la empresa que va a seleccionar los

el planteamiento que hace de elección del consejo de administración es absolutamente inverosímil yo creo que no sé qué comparativa

una cosa similar fuera digo en el ámbito de lo público en el ámbito de lo privado seguramente se eligen así y las empresas privadas así a los directores y a los consejeros buscando a los mejores profesionales seguramente este no es el camino adecuado para buscar un acuerdo en lo que tiene que ser un sistema de elección

de una radio televisión pública vasca seguramente aunque le pusiesemos a usted de director general mañana que reúne seguramente los principios de meritos y capacidad a usted o al que usted no se oponga

si mañana lo ponemos de director general al frente incluso con un consejo que también pueda elegir usted

al frente de la casa estoy convencido que no pueden cambiar

lo hemos visto estos últimos cuatro años los problemas de esa casa los problemas de e i te be no son unos problemas que se resuelvan cambiando el director general ni al consejo

las resistencias que ahí nos encontramos son mucho más profundas están mucho más

seguramente hay que repensar el modelo de televisión que queremos hay que repensar exactamente todos los errores que se han cometido hasta ahora

buscar consensos que no solucionan simplemente trayendo aquí una propuesta que se le ha ocurrido para cambiar al director general o al consejo nos decía bildu que ellos al consejo

no mandan parlamentarios que esos son puros y castos nosotros políticos no mandamos dice no han mandado a carmelo landa y a tontxu campos estos son como rosa díez que no son políticos o qué tontxu campos que fue consejero carmelo landa esos no son políticos como rosa díez pero bueno estamos de choteo o qué a quiénes están mandando al consejo no son políticos esos

tenemos muchos problemas que resolver desde luego tenemos seguramente muchas

complicidades que tejer porque esa casa ya no es

la casa al servicio del pnv no es ya le gustaría al pnv no es es una casa contaminada

que se les ha ido de las manos que necesitamos recomponer lo que tiene que ser

la dirección puede controlar la línea editorial de la casa y tenemos un problema gravísimo para el conjunto de la sociedad gravísimo que es

en cuáles de qué manera han entrado ahí al servicio de qué estrategias

por lo menos de muchos de ellos de los que están ahí imponiendo el miedo sobre una mayoría de plantilla de la que sí me fiaría pero no de los que quieren poner

una televisión vasca en la que no nos podemos sentir identificados los que no somos nacionalista hoy

señor maneiro ayer tuvimos ocasión de posicionarnos cada uno de los grupos sobre cómo vemos y cómo interpretamos e i te be

de cómo se está actuando y cómo se trabaja en el ente público

vasca y creo que tendremos que estar de acuerdo en que el problema no es el problema que ayer suscitamos que ayer manifestamos en esa comisión

a la directora general no es ese el problema y el problema es bastante más profundo el problema no se lo ha encontrado esa directora general antes había otra dirección elegida del mismo

motivación o tuvo más decisión a la hora de enfrentarse a los problemas que existen dentro de la casa tuvo también más éxito en ese problema pero concluimos creo yo en que el problema no es la forma de elección

en forma de proposición no de ley es en realidad una mezcla entre una proposición de ley de modificación de la declaración del ente y una oferta de empleo para cubrir unos puestos más a la manera de una empresa privada que otra porque usted llega a tasar los puntos en los que desde su punto de vista debe reformarse la ley

el procedimiento de modificación de ley se utilizó ya como usted expresa en la justificación de su iniciativa para las dos modificaciones anteriores

usted pretende que la ley incluya los requisitos precisos que siempre desde su punto de vista garantizarían la imparcialidad y profesionalidad del máximo responsable del ente y la profesionalidad

creo sinceramente que usted bajo el pretexto de asegurar la independencia política de los candidatos lo que pretende es fijar unos requisitos más propios de una oferta de empleo que de la elección

llegando al extremo de convertir a la comisión de control en un tribunal de selección no me parece que la selección de personas sea una labor que tengamos que desarrollar en esta cámara hablamos de una empresa pública la única en la que su máximo responsable es elegido por este parlamento

la creación de cuantas empresas públicas existen evaluamos en esta cámara y nos convertimos en tribunal evaluador y de selección de personas a cada candidato y candidata a dirigir cada una de estas empresas buscando alguna explicación a su propuesta

en un momento determinado con una designación o no se siente incluido en un acuerdo pienso que el camino que usted propone nos llevará más a un bloqueo en la elección tanto del director o directora general que a lograr esa independencia que usted proclama le recuerdo que hace cuatro años

al candidato propuesto por el gobierno y con su voto se sumo a la mayoría absoluta que ya existía entendemos que lo hizo porque compartía con nosotros que su perfil de periodista de larga trayectoria era una garantía de profesionalidad así lo defendimos nosotros

y fue elegido por una mayoría absoluta sin que usted pusiera ninguna pega al método de elección

en el que se ha tomado una posición en un momento y luego otra el señor madrazo por ejemplo

abogaba por una fórmula parecida a la que usted hoy nos plantea y en el dos mil cinco cuando el partido popular

como el que entonces protagonizó el señor ortuzar el mismo señor

rechazó aquella propuesta por eso le digo que creo que

de quien no se siente incluido en los acuerdos responde más

sobre lo que se quiere plantear y se lo digo desde la legitimidad de quienes hemos mantenido la misma postura cuando hemos estado en el gobierno y ahora que estamos en la oposición

a una reflexión profunda sobre el asunto pero advertimos que lo que se plantea hoy a debate no va a ser la panacea para garantizar la pluralidad de nuestra televisión pública en otro caso lo serían otros mecanismos

habría que estudiarlos con sumo detalle no vaya a ser que una demanda en apariencia limpia

y no puedan cumplir con su labor profesional voy a poner un ejemplo y a salirme del ámbito vasco por no herir susceptibilidades ustedes a radio televisión española con el mismo sistema de elección del director y de su consejo de administración con la misma ley en la pasada legislatura

como la mejor televisión en cuanto a pluralidad y hoy recibe críticas de todos los ámbitos políticos no es la ley señor maneiro no es la ley esto tiene que ver con la convicción profunda de que tengamos los representantes políticos sobre el modelo

en el modelo de designación del director del ente y es cierto que se puede

donde sí se exige la mayoría cualificada de dos tercios o tres quintos comunidades donde por cierto es habitual que haya gobiernos con mayoría absoluta de un partido sin embargo en un país como este

obligar a consensuar entorno a un candidato esa mayoría absoluta para una gestión que dura lo que la propia legislatura

como falto de garantías nosotros no tenemos problema en que pudiera ser una mayoría más cualificada se lo digo con toda sinceridad pero también nos preguntamos esa exigencia mayor

casi parece más apropiado en caso de plantearse una reforma sea para impedir largos periodos de interinidad como ya ha ocurrido como los que todos conocemos

pueda prolongarse indefinidamente durante varias legislaturas sin posibilidad de revertir

no le da la gana y señor maneiro desengáñese hacer un concurso público que esté supervisado por este parlamento de verdad

nuestra radiotelevisión eso es lo que deberíamos hacer que se cumpla la ley que tenemos vigente eso creo que sería el primer paso a dar que se cumpla la ley que tenemos vigente no nos oponemos a mejorar lo mejorable en el sistema de designación en ampliar consensos pero creemos que su iniciativa parte de premisas falsas usted y yo como los otros setenta y tres miembros de esta cámara representamos voluntades políticas también

sobre cómo debe funcionar un ente público de radiotelevisión por lo tanto

no debemos pretender convertirnos en examinadores de los candidatos a director general o de los miembros del consejo de administración porque

supeditado a nuestras posiciones políticas sobre el cómo vemos valoración del ente por eso le decía antes que lo importante es la posición política que tengamos la visión que tengamos sobre cómo debe funcionar un ente público

a nosotros nos parece que es temporáneo o por lo menos nos parece que no a lugar en este momento

por eso votaremos en contra de su propuesta y también el grupo eh bildu nos propone la segunda vez en cuarenta y ocho horas leo textualmente poner en marcha una nueva ley audiovisual parece que la panacea que para el señor maneiro es

hacer una selección por parte de esta cámara del director y del consejo de administración para ustedes

servicio público de radiotelevisión vasca se convierta en una nueva ley audiovisual

sobre si la mejora

tiene que basarse primero como he dicho antes en el cumplimiento de ley en una modificación de esta ley o en una nueva

de definirse sobre el asunto creo que sí puede haber razones generales que aconsejen un debate a fondo las hay de hecho de la situación no solo del ente radiotelevisión vasca sino del sector audiovisual en su globalidad pero no consideremos que el tema

del ente sea el motivo para establecer este debate creo que este es motivo de otro contexto de otro momento y no de un debate sobre la forma de elección

por lo tanto también nosotros votaremos en contra de la enmienda de totalidad del grupo eh bildu

perfectamente de acuerdo con que la dirección de e i te be como organismo multimedia órgano multimedia

citados en más de una ocasión desde esta propia tribuna profesional e independiente

ejecutando como es lógico profesionalmente su labor y dedicado y al servicio del conjunto de la sociedad vasca el sistema de elección

nuestra opinión un ajuste así lo hemos defendido nosotros anteriormente

fundamentalmente teniendo en cuenta la experiencia que hubo a inicios de este siglo a partir del año dos mil uno concretamente con

una situación de interinidad por parte del director general de la época el señor andoni ortuzar pero nosotros pensamos que el sistema actualmente en vigor es un sistema

es un sistema equilibrado entre las diferentes legitimidades que existen y es un sistema también sumamente exigente ya de por sí

este fue el primer parlamento y el primer ente multimedia de carácter público del conjunto del estado que estableció un sistema de elección

parlamento correspondiente en nuestro caso el parlamento vasco elección digo del director general de e i te be anteriormente como usted saben

de cada uno de los gobiernos de turno nosotros cambiamos ese sistema y por lo tanto no tenemos ningún problema en revisar en su caso si habría que cambiar pero insisto que el actual sistema a nosotros nos parece democrático

y muy exigente lo tenemos que elegir como ustedes bien saben al director general o a la directora general de e i te be por mayoría absoluta y ya eso de por sí creo que establece unas condiciones muy exigentes como digo y requiere un amplio consenso

eso es un valor pero tampoco podemos pasarnos de frenada tampoco podemos pedir nosotros para elegir al director general de un ente público en la medida en que lo único que podríamos provocar es precisamente el ahogo de ese sistema de ese mecanismo

la inaplicabilidad en la práctica de ese sistema por lo tanto por eso decía que también entre otras cosas es equilibrado fíjense si es exigente que

de e i te be es más exigente que la elección del propio lehendakari por esta cámara lo cual yo creo que nos da una medida del carácter yo creo que suficientemente serio que tiene ese sistema aquí

una de las cosas más importantes es que no ya solo el ente a la hora de desarrollar su labor

seamos muy conscientes y respetuosos con lo que dice el artículo tres de la ley de creación de e i te be un artículo que establece los criterios por los cuales e i te be debe de regirse a la hora de desarrollar su labor creo sinceramente que si nosotros fuesemos suficientemente respetuosos también el ente

si atendiéramos como digo a lo que establece el artículo tres de la ley de creación de e i te be creo que avanzaríamos realmente mucho

el modelo de elección siendo importante ya sea de la dirección general o del consejo de administración yo no me atrevería a decir que

es quizá lo más importante desde mi punto de vista no hay ley decreto

que garantice la independencia total en este caso de la dirección general de e i te be y el ejercicio honesto y profesional de una determinada labor lo único que en nuestra opinión puede garantizarlo es la actitud de los partidos políticos

en ese sentido si los partidos políticos actúan con la voluntad de respetar el trabajo honesto y profesional de la dirección de e i te be y de sus profesionales creo que estamos cerca de lograr ese objetivo décimos buscar eso no quiere decir se trata de un ente de carácter público que la dirección de e i te be y sus profesionales no estén sujetos a controles pero en nuestra opinión debemos de aprender a respetar

sincera y honestamente lo que es un medio de comunicación lo que es una empresa informativa y lo que supone y significa la labor periodística y creo que en este ámbito

un trecho importante por recorrer cuál es la labor cuál es la función de la profesión periodística y del ejercicio de la profesión periodística

es más en mi opinión la actitud de los partidos políticos de respetar insisto la profesionalidad

así como la profesionalidad de los trabajadores del ente

también no lo obvio como es evidente la profesionalidad de los propios profesionales que trabajan en el ente

la profesionalidad de la dirección y de los profesionales que trabajan en el ente y los profesionales del ente trabajar y desarrollar su labor de una manera honesta y profesional

por lo tanto en nuestra opinión buena parte de esta discusión tiene que ver mucho con la cultura política con las actitudes políticas y creo que en ese sentido tenemos un camino para recorrer

gracias presidenta decía

comparte los objetivos señalados en nuestra iniciativa pero que lo que nosotros proponemos no es suficiente y estamos de acuerdo lo que nosotros proponemos seguramente no es suficiente

que los miembros del consejo de administración no son entendidos en la materia cosa que es rigurosamente cierta

no quisimos estar en el consejo de administración de e i te be independientemente de que tuviéramos derecho o no

y por esta razón hemos renunciado también a estar fuera de los consejos de administración de otras televisiones autonómicas hemos renunciado expresamente a ello para

lo hemos hecho en diferentes lugares esta es nuestra postura y por lo tanto nuestra coherencia se dice que el problema es más profundo y es algo que han repetido otros portavoces el problema es más profundo y nosotros no lo negamos pero consideramos

del director general y de los miembros del consejo de administración aportaría mucho para lograr esos objetivos el grupo popular también comparte los objetivos pero define nuestra propuesta como inverosímil cuando lo que nosotros proponemos es un sistema semejante al sistema que se utiliza

y elección del director general del ente y de los miembros del consejo de administración por los parlamentarios por los representantes de los ciudadanos pero con un concurso previo me parece que es una propuesta más que razonable para lograr

ampliar los votos necesarios para que pudieran ser elegidos si hubiera más consenso y más pluralidad

público para que efectivamente el director general de e i te be y los miembros del consejo de administración no sean representantes de unos partidos políticos sino que efectivamente puedan ser neutrales

en la materia decía el señor oyarzabal que los problemas en e i te be son más profundos y que

correcto pero qué problemas más profundos por ejemplo señor oyarzabal hay en telemadrid

o lo que realmente ocurre en esa televisión es que ustedes la utilizan para tergiversar la información manipularla y defender sus objetivos políticos

qué problemas internos qué resistencias hay en telemadrid qué resistencias

y como siempre no plantea nada que es la postura habitual de los partidos viejos y en concreto del partido popular criticar lo que se hace y lo que no se hace y lo que se ha hecho

pero no proponer nada y algo también habitual en esta cámara que cuando upyd propone una propuesta que es se dice que era demasiado concreta y cuando se propone una propuesta genérica se dice que es excesivamente genérica pero la realidad de los hechos es que ustedes no han propuesto ninguna enmienda

cosa semejante con el grupo socialista con una novedad que

por no estar en el acuerdo absolutamente falso y fuera de la realidad insisto en otras partes de españa hemos renunciado expresamente a formar parte

y hubiera renunciado y seguiré renunciando a estar a formar parte del consejo de administración de e i te be

háganlo ustedes sería también un paso interesante pero no proponen nada proponen dejarlo todo como está

por razones formales vota en contra de nuestra iniciativa propuesta efectivamente excesivamente no obstante comparte los principios señalados aunque apunta que el sistema de elección necesita un ajuste aunque no concreta cuál cuál es su propuesta cuál es que ustedes propondrían salvo esto que usted dice de la actitud de los partidos políticos y que haya una mayor cultura política cosa que lógicamente compartimos en todo caso yo

no votan a favor de esta iniciativa y es algo muy sencillo de entender porque quieren seguir controlando las radios y las televisiones públicas que ya controlan

aquellas que en este momento no controlan esta es la realidad de los hechos y si ustedes votaran a favor de esta propuesta de upyd evidentemente tendrían un problema en andalucía

en cataluña o en otras partes de españa porque lo que han hecho ustedes los partidos viejos durante la democracia

las televisiones públicas también la nacional para tratar de vender su política y tergiversar y manipular los hechos y ustedes no quieren

de esta iniciativa porque quieren seguir controlando las radios y las televisiones que ya controlan y porque aspiran en un futuro más o menos cercano a controlar aquellas que no controlan esta es la realidad de los hechos porque ustedes no proponen nada novedosos quieren dejarlo todo como está y por lo tanto

en e i te be lo que hacen falta son propuestas novedosas que ya se han experimentado en otros países y que han venido funcionando bien y que

es lo que demuestra que falta cultura política y cultura democrática y que siguen aspirando a utilizar los medios de comunicación y ponerlos a su servicio la realidad de los hechos me parece una propuesta más que razonada que ya se ha utilizado ya digo en otros países y que ha funcionado bien y que se trata de lograr esos objetivos es una propuesta que evidentemente

resolvería todos los problemas pero que consideramos que es imprescindible no es la panacea pero sería un paso fundamental para lograr tener unos medios de comunicación rigurosos profesionales objetivos plurales que es hemos tenido en euskadi lo que nunca hemos tenido en euskadi ni en madrid ni en la comunidad valenciana ni en andalucía

y no los hemos tenido porque ustedes han venido gobernando gracias eskerrik asko maneiro jauna

señor maneiro mire creo que la propuesta que hoy trae aquí no tiene sentido usted sabe perfectamente que la propuesta que hoy trae aquí

no es la solución a los problemas que tiene e i te be ha tratado de soltar aquí para todos

una televisión que dice si controlamos nosotros es una televisión en la que me suelen insultar bastante a menudo y en la que suele aparecer sobre todo rosa díez yo cada vez que

insulta al pp vasco pero no sé si se refiere a eso

creo que e i te be de verdad necesita que todos hagamos una reflexión

y desde luego el partido popular quiere que construyamos

acuerdos suficientes para que esta sea una televisión de todos que busquemos

la bbc yo hoy mi grupo votaba su propuesta el sistema de elección de la bbc si tuviesemos una televisión parecida a la bbc por supuesto

no puede usted empezar la casa por el tejado y usted sabe perfectamente que si hoy cambiamos al director general por el sistema que usted plantea porque el consejo yo no sé si se ha leído la ley es que el consejo no es ejecutivo es que usted quiere hacer un planteamiento de consejo de administración cuando el consejo prácticamente no tiene atribuciones

la responsabilidad ejecutiva reside en la dirección general y en su equipo

que me dé un nombre lo ponemos mañana al frente de la etb y usted no puede cambiar ni el mapa del tiempo sabe lo que le digo sabe

y nosotros lo que hoy queremos transmitir lo hemos transmitido ya lo hemos transmitido en el consejo y lo hemos transmitido en la comisión

a poner a dar nuestro respaldo a poner a los consejeros que nos representan en nombre de este parlamento al servicio de una mayoría que trate de cambiar las cosas en e i te be para hacer de esa televisión una televisión que respete el pluralismo de nuestro país que no sea una

de una ideología ni al servicio de una estrategia política que sea una televisión que responda a los criterios que usted aquí defendía junto con nosotros de una televisión veraz que responda también a criterios de profesionalidad e imparcialidad queremos una televisión de verdad que sea para todos y con la que todos

identificados esta no es la que tenemos hoy desde luego

buscarán acuerdos unos los que controlan por abajo la casa otros la controlan por arriba el apaño que suelen buscar es oiga no me toques las narices aquí no te las toco yo siempre acuerdan el pimpampum es el pp siempre eso es fácil acordar en etb siempre se ponen de acuerdo

y para hablar de otras cosas para desviar la atención de las cosas que pasan aquí para eso se pondrán de acuerdo nosotros ponemos nuestros votos en etb aquí y en e i te be

para eso sí hoy eso no lo resolvemos con su propuesta eskerrik asko oyarzabal jauna

yo creo que de lo que se trata no es tanto de dar un salto en el vacío como usted propone

compaginar lo que es la gobernabilidad de una empresa pública y la responsabilidad que en esa gobernabilidad tenemos tanto el parlamento como el gobierno vasco con la

con apoyar que los principios de objetividad e imparcialidad

se mantenga en los entes públicos

por si no ha quedado claro con la misma ley con el mismo sistema de elección dos direcciones de televisión española en este caso de radio televisión española una ha sido

y la otra ampliamente denostada yo creo que ese es el ejemplo de que no es el sistema si no que es algo más profundo algo más importante que

negamos a discutir pero que no se resuelve con una medida como la que usted propone en este momento o simplemente con una medida

bai eskerrik asko presidente andrea yo cuando me refería a la necesidad de hacer un ajuste en la ley de creación de e i te be de cara a la elección del director general me refería a intentar superar la situación de interinidad que se vivió entre el año dos mil uno y dos mil ocho

de hecho es una propuesta que nosotros trabajamos aunque luego pasó lo que pasó y de eso

usted firmó un acuerdo usted firmó un acuerdo que luego no lo cumplieron pero bueno eso es otra historia cuando me refiero a cultura política señor maneiro me refiero precisamente a lo que

actitudes que mantuvo también ayer no se pueden mantener actitudes políticas basadas en la pura soflama en la soflama extremista y radical

y sin demostrar elevar a la categoría de soflamas algunas ideas que usted no demuestra sino que más o menos bueno pues al día siguiente sabe que

a intentar acaparar una parte de protagonismo de la vida política de este país esas son actitudes que yo creo que van en contra de una cultura política aplicadas en este caso a e i te be que no favorecen a e i te be y a esos me refería qué es lo que ha cambiado señor maneiro qué ha cambiado en estos momentos para hacer la propuesta que usted hace

usted decía ante una propuesta relativamente similar entonces realizada por ezker batua en la persona del señor arana decía

a que en un momento adecuado pero con calma sin precipitaciones y con coherencia podamos abrir este debate

pero insisto leo literalmente que este debate debe realizarse sin precipitaciones y sin prisa y añadía entendemos sinceramente que este no es el momento apropiado para presentar esta propuesta

la consideramos precipitada fuera de tiempo y abocada al fracaso

en cuatro años y dos apuntes la tensión o cierta discusión entre los medios públicos de radiodifusión de televisión en fin multimedia y los poderes públicos y los partidos políticos es ciertamente algo relativamente normal y natural pero siempre que se lleve

esa cultura política que estoy yo reclamando respeto a la profesionalidad de los medios de comunicación de sus dirigentes y de los profesionales

yo le diría que la independencia de la bbc está basada básicamente en su sistema de financiación y no tanto en la manera de elección

sino en su sistema de financiación eskerrik asko barkatu